jasotzeko aukera gisa hartzen diren langileak dira askotan no es fácil la situación que viven las personas con discapacidad o diversidad funcional en el dos mil doce se ha reducido en un veintitrés por ciento las contrataciones de estas personas y solo

las que sufren con mayor intensidad la situación de discriminación ikuspuntu horretatik

gracias presidenta volvemos a debatir en esta cámara los recortes sociales impulsados por uno u otro gobierno y en este caso

no sé si exclusivamente o casi en los recortes sociales que ha venido impulsando el gobierno central en los últimos tiempos parece ser escuchando a los diferentes portavoces que todos estamos en contra

incluso aquellos grupos que han impulsado y que están impulsando diferentes recortes sociales allí donde vienen gobernando esta es la realidad de los hechos podemos recordar no solamente la política económica absolutamente disparatada del señor sino también sus recortes sociales y podemos recordar lógicamente porque son presente los actuales

pero también podríamos recordar los recortes sociales impulsados por el anterior gobierno vasco o incluso por las actuales diputaciones forales

ustedes han venido gobernando y gobiernan por lo tanto ha habido recortes sociales se han impulsado recortes sociales y todos ustedes en los últimos tiempos han aplicado esas políticas es significativo en concreto

del partido popular haya planteado una enmienda con la que también se opone a los recortes no sé si a los recortes

los recortes impulsados drásticos salvajes del gobierno de rajoy en todo caso

a la humanidad que representa ponerse al lado de los que peor lo están pasando con esta crisis entre ellos las personas con discapacidad

en este debate lo cierto es que se ha avanzado mucho en los últimos años en la integración y en la prestación de servicios a las personas con diversidad funcional gracias a la presión que han ejercido las asociaciones que los agrupan y a la creciente concienciación social para sus derechos por eso no podemos permitir que ahora y con la excusa de la crisis se recorten esos avances y se vuelva a situaciones pasadas es decir que volvamos

de estas personas como decía el gobierno central ha impulsado recortes pero tampoco podemos olvidar que las diputaciones forales han venido impulsando recortes tampoco podemos olvidar que el gobierno vasco redujo el siete por ciento de las aportaciones a la renta de garantía de ingresos que cobran muchos discapacitados vascos y que el ejecutivo anterior también

importante las ayudas económicas a los centros especiales de empleo que dan trabajo a miles de personas con diversidad funcional por lo tanto este es el escenario global en el que nos encontramos políticas disparatadas del inolvidable señor

gobierno recortes del gobierno central actual recortes del gobierno vasco anterior recortes de las actuales diputaciones forales

pero claramente mejorable y de muy difícil aplicación práctica que también hay que poner encima de la mesa o el desarrollo pendiente de la ley vasca de servicios sociales esos son los problemas fundamentales que perjudican al conjunto de los ciudadanos vascos en todo caso nosotros queremos

de los colectivos de personas con discapacidad para que no se dé ni un paso atrás en sus derechos y que se pare cualquier tipo de recorte los del gobierno central pero también los recortes de las diputaciones forales no admitimos los recortes

pero tampoco admitiremos que se cierren o recorten servicios sociales ni que se ataque el empleo protegido

en el trabajo protegido es realmente dramático por eso como digo apoyamos y apoyaremos todas las acciones encaminadas a mantener programas y prestaciones económicas que reciben las personas con discapacidad incluso en la situación actual de crisis económica pensamos que es perfectamente posible

el estado del bienestar e impulsar otro tipo de políticas que no son las que se han aplicado en los últimos años en el conjunto de españa y tampoco en euskadi y que harían perfectamente posible

desgaituak kalera irten ziren rajoyren gobernuaren murrizketen kontra los medios estatales del día tres de diciembre un solo día antes

recogían en titulares la mayor manifestación de personas con discapacidad celebrada hasta ahora

miles de personas protestan por el recorte a las ayudas a discapacitados y dependientes beraz

hay que ser rigurosos con el gasto y con las propuestas que se plantean máxime

bestalde hain premiazkoa bazen fondoaren sorrera zergatik ez zuen aurreko gobernuak egin reitero que cuando se presentó la iniciativa el señor

en otras cosas bien que ha agilizado los trámites pertinentes del gobierno anterior para dejar cerrados asuntos beraz

los dos primeros puntos de la transaccional manifiestan el apoyo de la cámara

a lo largo de los años y piden a las administraciones públicas vascas

plena e independiente respecto a la petición de la primera parte del punto tercero es reflejo de la propia ley de servicios sociales que en su artículo primero dice

el derecho a las prestaciones y servicios sociales mediante la regulación y ordenación de un sistema vasco de servicios sociales de carácter universal

los poderes públicos garantizaran la disponibilidad y el acceso a las prestaciones y servicios regulados en el catálogo de prestaciones y servicios del sistema vasco de servicios sociales por lo tanto

con el compromiso de que haremos todo lo posible para obtener también la transferencia de las políticas pasivas de empleo recogidas en el estatuto para regular directamente

la segunda parte de este punto pone en valor el trabajo que han venido realizando las organizaciones del tercer sector a favor del colectivo de personas con discapacidad pidiendo a las distintas administraciones que continúen colaborando con las mismas y con las asociaciones y entidades representativas de este colectivo

gizarte zerbitzuen erakunde arteko organoa indartzea eskatzen diogu gobernuari para conseguir un desarrollo coherente y armónico de los servicios sociales en todo el territorio autonómico y con la máxima colaboración y participación de todos los ámbitos institucionales con competencias en materias y servicios sociales

que en los temas sociales la coordinación y consenso de todas las sensibilidades políticas y sociales y de todas las instituciones con competencias en la misma

y no cesaremos en el empeño de conseguir los acuerdos más amplios posibles en este ámbito besterik ez erdibideko zuzenketa sinatu ez duten taldeei baiezko botoa

responder de forma breve a todo lo que aquí se ha dicho decía la señora lópez de ocariz que compartimos las reivindicaciones y los lemas de las personas con discapacidad compartir es una cosa

de palabra y de hecho las cuestiones son diferentes menciona

en esta cámara nos estamos empezando a acostumbrar a oír del partido popular que todo lo que pasa en este país es culpa

dice que somos torpes e incorregibles mire se lo voy a decir de corazón prefiero ser torpe e

que estar en todos los medios de comunicación como está ahora el partido popular con las cuestiones que están pasando y le aseguro que yo no aparezco en las listas del señor bárcenas y se lo digo de corazón y en este momento no solamente hablo en nombre del grupo parlamentario en nombre de muchas personas con una discapacidad con una dependencia y sus familias y yo creo que cualquiera de las personas que estamos en esta cámara estamos en esa situación

nos critica que hemos estado tres años y siete meses en el gobierno efectivamente y apoyados por ustedes

cuando el gobierno socialista ha mantenido el estado de bienestar

hemos dado una lección de que hay otra manera de gobernar manteniendo la educación la sanidad y las políticas sociales y vuelvo a repetir ustedes nos han estado apoyando durante tres años las cosas que yo he expuesto aquí no las digo yo las dicen los colectivos que representan a las personas con discapacidad y sus familias y dice el fermi el día veintisiete de septiembre del dos mil doce reducciones presupuestarias agresivas supresión de programas consolidados durante mucho tiempo retrasos e impagos generalizados

por delegación de las administraciones desaparición de entidades por falta de financiación aumento de la exclusión y la pobreza son la tónica general en todos los territorios con la consiguiente destrucción

y sus familias esto lo dice el fermi además ya le he dicho

que los resultados publicados por el observatorio estatal para la dependencia sobre el dos mil doce hablan no solo de un retroceso sino de una derogación encubierta de la ley

lo dice el observatorio estatal para la dependencia

dice usted que la proposición original no tiene nada que ver con la transada mucho más rica hemos intentado

para enriquecer el texto y así lo hemos hecho podría usted leer la enmienda que metió y creo que habla por sí solo

que apoye el texto transado en cuanto a lo que se ha aludido de los recortes

del gobierno socialista en la anterior legislatura ya lo dijo la señora sánchez en el pleno anterior que es reducción del siete por ciento de la rgi fue una posición política forzada por la coyuntura económica

y que nosotros ya proponíamos durante un tiempo una reforma fiscal para aumentar los ingresos que es el problema que tenemos

de esta cámara nos apoyo por otro lado en lo que se refiere a lo dicho por la señora

en nombre de eaj pnv le puedo decir que nosotros no hemos recogido más que lo que dice eaj pnv en su programa electoral culminaremos el desarrollo integro de una cartera de servicios para la promoción y atención a la dependencia

avanzaremos en el modelo mixto de colaboración público privada con especial atención al tercer sector pondremos a disposición del sistema vasco de servicios sociales los recursos

y van a intensificar la colaboración interinstitucional que permite tener un sistema vasco de servicios sociales homogéneo para toda la comunidad que es lo que ha recogido el grupo

hemos estado hablando con eaj pnv y con eh bildu agradecemos además la tónica de la conversación y el diálogo que hemos llevado y lo que se ha tratado el texto y por lo tanto desde este escaño tengo que agradecer lo que finalmente hemos acordado

el resto de los grupos nada más muchas gracias eskerrik asko sarasua anderea euskal talde popularraren

le ha fallado la memoria el partido socialista ha sido condenado por financiación ilegal el partido popular no señora sarasua son ustedes

legitimados para gobernar los únicos en posesión de la verdad la verdad absoluta los más sociales señora sarasua

recortando del setenta y cinco por ciento al cincuenta por ciento la aportación del salario mínimo interprofesional para cada trabajador

ustedes estaban recortando porque eso es recortar bajar un veinticinco por ciento con la transferencia de políticas activas

del setenta y cinco por ciento y no lo han hecho no lo hicieron

de lo que dicen ustedes de los recortes del gobierno de españa y en esta cámara presentando iniciativas en contra de los recortes

en época electoral sacan una nueva convocatoria del veinticinco por ciento restante

y que les van a dar un diez por ciento pero señora sarasua esto es un buen gobierno esto es un buen hacer

este recorte por ejemplo para indesa el centro de álava le correspondía recibir por sus setecientos trabajadores ochocientos veintiuno mil euros y va a recibir quinientos mil eso que es

imagínese lo que supone para los centros de bizkaia y gipuzkoa para gureak

tienen muchísimos más trabajadores pero además fruto de su nefasta gestión que han llevado desde lanbide existen retrasos muy importantes en el pago de ayudas al mantenimiento de empleo y el veintiocho de enero de dos mil trece se han pagado los meses de junio

julio y agosto de dos mil doce quedan pendientes septiembre octubre noviembre extra de noviembre y diciembre señora sarasua

esto es gestión y lo que están generando es importantísimas tensiones de tesorería y los consiguientes problemas

se van a mantener las prestaciones pero

y decir que tenemos suerte que las diputaciones de álava de una u otra manera puedan seguir manteniendo las prestaciones que se estaban dando hasta ahora y que no hablemos de recortes cuando lo que están haciendo es un esfuerzo importantísimo

este área tan sensible señorías para el grupo popular las acciones para desarrollar las prestaciones y servicios a favor de las personas con discapacidad y sus familiares se deben sustentar en cuatro grandes objetivos garantizar la sostenibilidad proteger a las personas

simplificar y clarificar los procedimientos y asegurarse de que las prestaciones

reales de las personas en definitiva se trata de alcanzar una dependencia justa solidaria sostenible equitativa

y eficaz señora sarasua ustedes basan su éxito en la agitación

y la responsabilidad eskerrik asko

el grupo popular trae a esta cámara un asunto relacionado con la incorporación en las escuelas infantiles del consorcio haurreskolak del tratamiento equilibrado de las dos lenguas oficiales de nuestra comunidad el euskera

los objetivos del consorcio haurreskolak son desde su inicio en primer lugar la atención educativa integral

en segundo lugar la educación social la atención social a las familias en el ámbito de la conciliación familiar

de la vida laboral además estas escuelas infantiles del consorcio

pretenden promover una educación preventiva y compensatoria aquella que trata de salvaguardar y que busca la equidad además

la propia página web del consorcio de favorecer e impulsar desde el inicio

las condiciones adecuadas para garantizar un bilingüismo efectivo contando con las dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma vasca el castellano y el euskera asimismo también trata de estimular

atendiendo por ello a todas las capacidades al desarrollo de todas las capacidades de los niños y niñas aquellas que tienen que ver con sus capacidades físicas afectivas intelectuales o sociales

escritos del consorcio figura entre otras señaladas entre sus finalidades posibilitar ese desarrollo integral

habla de formación y de socialización se menciona las potencialidades a desarrollar las afectivas las senso motoras las cognitivas

relacionales o las sociales y vuelve a remarcar otra vez creo que hasta cuatro veces

que forman parte de los fundamentos y del proyecto educativo del consorcio haurreskolak

la garantía del bilingüismo y el contacto de los niños y niñas equilibrado con las dos lenguas el euskera

ese proyecto educativo el de las escuelas infantiles del consorcio haurreskolak recoge en lo relativo al tratamiento lingüístico que

y lo quiero leer expresamente en mil novecientos veintitrés

de educación de luxemburgo defendieron el derecho a la enseñanza en lengua materna dice también así el propio escrito de

del consorcio haurreskolak el derecho a la educación en la lengua materna

y protegido por leyes en muchos países la unesco proclama que los niños y niñas tienen derecho a aprender en su lengua en la lengua materna independientemente de cuál sea esta así mismo defiende la necesidad de promover una actitud positiva hacia el bilingüismo desde el respeto a la lengua familiar de los niños

de garantizar el derecho efectivo a las familias de nuestra comunidad a que también en las escuelas infantiles en un servicio que impulsó y trató de garantizar en el ciclo cero dos años el gobierno a través también de la coloración con los ayuntamientos y otras instituciones

pues por ello una vez más de traer este asunto para que se cumpla porque hemos aprobado aquí

un texto que puede ser similar al que podamos aprobar hoy pero la realidad nos hace tener que recordar hoy aquí que eso

y seguramente como se dice muchas veces el papel lo aguanta todo pero se trata de cumplir de cumplir de hacer realidad lo que dice ese papel y sobre todo

el mandato de esta cámara que es hacer cumplir ese derecho de las familias siempre hemos aceptado desde el grupo popular siempre hemos aceptado

en las escuelas infantiles incluso hemos aceptado que tenga una presencia determinante pero que la lengua materna del ochenta por ciento de los vascos es el castellano y que no es razonable no es razonable por mucho que el euskera sea la lengua principal

no es razonable que el castellano esté desaparecido en todas las escuelas infantiles pertenecientes al consorcio haurreskolak en ese consorcio tiene responsabilidades el gobierno no es razonable

arrincone y que se expulse de un consorcio público a una de las dos lenguas oficiales de nuestra comunidad creemos además

también de introducir lo creíamos y por eso lo hemos hecho de introducir también la incorporación temprana del inglés creemos que aunque en el ciclo cero dos se hable solo de oportunidades en actividades etcétera

del niño la introducción progresiva en la segunda etapa para niños de uno o dos años

muchas escuelas infantiles privadas o muchas aulas de dos años en centros concertados de

posible y es posible que sea algo recogido también por el consorcio haurreskolak no ha sido posible buscar en esto un acuerdo y no ha sido posible especialmente encontrar respaldo a la incorporación del inglés por parte del partido nacionalista vasco nos ha sorprendido porque hace

el propio pnv presentó una iniciativa una enmienda que compartía con nosotros la necesidad o la oportunidad de incorporar el inglés en una parte de ese ciclo de las escuelas infantiles

no ve necesario esa incorporación progresiva del inglés aunque solo sea para de alguna manera familiarizar a los niños en algo que se van a encontrar

una incorporación temprana del inglés y nos parecía razonable que el consorcio haurreskolak las escuelas infantiles públicas pueden competir en igualdad de condiciones con otras privadas o con las aulas

esa posibilidad nosotros lo único que queremos más allá de haber tratado de cerrar un acuerdo y de haber cerrado un acuerdo con el partido nacionalista vasco que al fin y al cabo es quien va a tener a partir de ahora la responsabilidad de hacer cumplir esto porque

del departamento de educación del gobierno vasco hemos querido apartando eso que nos diferenciaba hemos querido aparcar la incorporación del inglés para centrarnos en lo importante que se respete realmente ese tratamiento

al partido del gobierno para comprometer en el cumplimiento

de este mandato de la cámara algo que no hizo el gobierno anterior y por eso a pesar de que en octubre del dos mil nueve aprobamos un texto similar hoy siguen

personal de comprobarlo hemos llamado a escuelas infantiles para interesarnos de cual era su tratamiento lingüístico nos han explicado de manera expresa a mí personalmente y a otros colaboradores míos lo hemos hecho hasta en ocho centros

de bilbao de otros municipios donde la lengua de las familias

y nos han explicado que por supuesto que solo se habla a los niños en euskera que solo

que el castellano no está en la escuela porque por supuesto nos interesábamos cual era la presencia del euskera nos dijeron que no nos preocupásemos que no había ninguna presencia del castellano

que ellos se preocupaban que no tuviesen ningún contacto y que todo se hacía en euskera eso

y vamos no se trata de que traigamos aquí las pruebas concretas de a qué escuelas nos referimos pero yo creo que ya es hora de que las cosas que se aprueban en este parlamento el gobierno se encargue de hacerlas cumplir sobre todo cuando estamos hablando de

jaun andreok señor oyarzabal esperaba de usted en aras a la economía de la política y a la eficiencia en el funcionamiento

retirara su propuesta y lo esperaba de usted porque efectivamente su propuesta conteniendo un objeto de la discordia como era la introducción del inglés no en la segunda etapa de educación infantil señor oyarzabal sino en la primera etapa de educación infantil

de niños de cuatro meses a veinticuatro meses porque a partir de los dos años ya están en las escuelas colegios comunes que es donde se introduce el inglés

el debate lingüístico sobre la introducción del inglés en las haurreskolak

por pactar inmediatamente con el partido nacionalista vasco así como los deseos fervientes del partido nacionalista vasco por no quedarse solo

una propuesta que primero nada tiene que ver con su discurso aquí en este momento porque usted entender lo que buscaba ahora con su enmienda transaccional más un ejercicio de sumisión señor oyarzabal que un ejercicio de transacción he de decirle lo que usted buscaba según ha dicho usted aquí es que el partido del gobierno

un discurso recurrente en esta cámara como es que en el primer tramo de educación infantil

tuvieran exposición a las lenguas cooficiales con respeto a la lengua de origen

y se atendiera a sus necesidades con el fin de

su creatividad y ciertamente que se sintieran a gusto

porque esto es lo más importante la conexión emocional de la criatura con la escuela esto es lo que hay que lograr y desde luego hay que lograrlo en un ambiente grato familiar en un ambiente en el que señor oyarzabal no sé lo que le habrán contestado las escuelas que usted ha conectado pero también hay una introducción por eso creo que usted ha sido muy taimado y ha transado muy rápido

palabras en inglés colores en inglés a esa edad

no en todas las haurreskolak pero sí en muchas sí en muchas azken finean señorías hitz egiten ari gara

este debate es recurrente estamos todos

precisamente al valor añadido que tenía su propuesta que era el debate

nada más señorías muchas gracias pero realmente yo creo que estos debates
deberían ser mucho más cortos muchas gracias eskerrik asko

eta horrek zer esan nahi dau pues que el departamento competente

a impartir en cada centro teniendo en cuenta la voluntad de los padres o tutores

oyarzabal siendo los objetivos y los contenidos de enseñanza adecuados para las necesidades de los alumnos

incluidos los relacionados con la aplicación de los modelos de enseñanza bilingüe vigentes en el centro ildo honetan haur hezkuntzako kurrikuluma zehaztu eta

este grupo no se muestra contrario a que se promueva la introducción progresiva del inglés o en su caso de otra tercera lengua pero siempre y cuando no suponga una recarga cognitiva para los menores de tan temprana edad existen numerosos estudios por mencionar varios los de jasone ceroz catedrática de filología inglesa de la upv

profesor de psicopedagogía de la universidad de roma que aseguran que no es conveniente introducir una tercera lengua en la educación infantil de cero a dos años

el segundo ciclo de la educación infantil en este caso de tres a seis no es recomendable la introducción de una tercera lengua y que debería exigirse

por ello hemos llegado a una enmienda transaccional con el partido popular en la que no abordamos ese segundo punto que su grupo planteaba puesto que creemos que se trata de

más profundas pero sí hemos logrado este acuerdo en el resto

por entender que de este modo se garantiza esa responsabilidad que he mencionado anteriormente

gracias presidenta efectivamente

o incluso prácticamente idéntico lo mantuvimos a finales del año dos mil nueve

si no recuerdo mal aunque tampoco hablo de memoria porque efectivamente lo comprobé

que finalmente se ha firmado ya digo que si no recuerdo mal es básicamente la misma que se firmó hace tres años y medio y que también firmó el grupo socialista

no ha firmado esta enmienda transaccional que efectivamente creo que todos compartimos quizás sea por coherencia porque efectivamente el grupo socialista durante sus tres años y medio de gobierno esto que aquí se dice y que es tan razonable pues se pueda cumplir quizás sea por eso que finalmente no ha firmado o quizás sea por otras razones que no llegamos a entender en todo caso nosotros compartimos lo que se dice ahí y

oyarzabal planteaba al menos en el primero de los puntos porque respecto a la introducción del inglés sí que es cierto que estamos hablando de una etapa

debería ser como mucho iniciática de base o de iniciación estamos hablando de niños lógicamente de cero a dos años y finalmente no se ha introducido el trilingüismo que proponía el grupo popular y creo que me parece bastante acertado bastante prudente efectivamente hay estudios técnicos sobre

nos parece una iniciativa que no es en absoluta superflua o innecesaria como la señora celaá ha planteado me parece que es una iniciativa correcta y necesaria porque lo que aquí plantea no podemos olvidarlo sigue sin cumplirse no se cumple en euskadi lo que aquí se plantea que por mucho que la legalidad vigente lo defienda o los diferentes decretos en vigor lo cierto es que el castellano no está presente

y es prácticamente imposible encontrar un haurreskola donde efectivamente

el euskera es por lo tanto prácticamente la única lengua en las haurreskolak y nosotros pensamos que esto hay que cambiarlo y por lo tanto todas las iniciativas que se planteen para poner este asunto encima de la mesa lógicamente las apoyaremos cuál es el problema esto que aquí se plantea no se cumple tantos años después no se cumple no lo cumplieron los gobiernos nacionalistas y tampoco lo cumplió el gobierno socialista no dijeron tampoco nada el grupo socialista y tampoco el grupo popular durante la pasada legislatura el grupo popular se mantuvo de brazos cruzados más allá de presentar de vez en cuando

para obligar al gobierno a que efectivamente cumpliera esto que aquí se dice por lo tanto pensar que este nuevo gobierno nacionalista vaya a cumplir aquello que ustedes no hicieron posible que se cumpliera

me parece un deseo que nosotros compartimos pero bastante alejado de la realidad en todo caso nosotros nuestro voto puede ser bastante útil depende para qué

este asunto lo pondremos encima de la mesa y se lo recordaremos al gobierno como un asunto absolutamente fundamental los niños a dos años sus padres tienen perfecto derecho a que se les hable también en castellano cosa que a día de hoy no ocurre efectivamente ustedes no hicieron lo que debían hacer durante sus tres años y medio de gobierno

respetando en todo caso la lengua materna de los niños

muchas gracias presidenta bien ahora vamos a leer lo que decía la enmienda del dos mil nueve y lo que dice ahora la enmienda porque hay algunas cosas que chocan al

sobresalía más antes de llegar al gobierno en el año dos mil nueve parece que después de su paso por el gobierno

viene aquí con un poco de vuelta de todo y seguramente para que pase desapercibido

votar hoy aquí no firmar lo que firmaron en el año dos mil nueve

no quiere reconocer su responsabilidad en este asunto porque quién ha dirigido el departamento en estos años

por qué no se aplica el mandato de esta cámara por qué no se aplica en la realidad

qué seguimiento han hecho ustedes cuál ha sido su acción

de inspector para qué está la inspección educativa tengo que hacer yo un programa de investigación para que me cuenten en cada escuela

el mandato de este parlamento bueno pues eso es lo que usted tiene que explicar el objetivo de esta propuesta no era ir más allá para qué voy a perder el tiempo en introducir la tercera lengua si ustedes no son capaces

el tratamiento de las dos lenguas cooficiales con lo cual yo casi me doy por contento si me voy de aquí con un compromiso

de que las dos lenguas oficiales tengan presencia en las escuelas infantiles públicas

público con dinero que pagamos todos de los impuestos de todos los vascos y he repetido una frase suya dicha en esta tribuna señora celaá el ochenta por ciento de los vascos

simplemente estoy pidiendo que se respete eso eso no es hablar de imposición como decían desde bildu y desde luego el pnv nos ha dicho aquí

que se tendrá en cuenta la realidad socio lingüística

como le decía antes el papel lo aguanta todo pero desde luego eso no ha sido lo que han hecho los gobiernos en estos años no han respetado la realidad socio lingüística de cada zona han aplicado una tabla rasa

si las escuelas infantiles las de primaria las de secundaria se encontraban en el goierri guipuzcoano en la margen izquierda

con realidades socio lingüísticas radicalmente distintas se han aplicado

similares las de la imposición sí de las que hablaban también por aquí

tenemos una oportunidad tenemos un acuerdo que responde a una voluntad que estas escuelas públicas recojan ese tratamiento de las dos lenguas

a que en función de esa realidad socio lingüística preexistente en cada lugar el euskera tenga una mayor relevancia que sea determinante en esa actividad que rodea a los niños en esa etapa pero desde luego que no se

de la escuela las incoherencias además le voy a decir el psoe decía además

es muy importante respetar la lengua materna por dos razones porque da seguridad al niño

y el vínculo afectivo algo fundamental en esa etapa para el niño o la niña con la educadora esto lo decía el representante del grupo socialista en esta tribuna señor reyes cuando debatimos esta cuestión y le voy a recordar para terminar a la representante

que lo que firmamos en el dos mil nueve decía el parlamento vasco insta al departamento de educación a incorporar suficientemente el tratamiento de las dos lenguas oficiales

haurreskolak respetando en todo caso la lengua materna de los niños y niñas incorporaba esto

pues el grupo socialista que ahora no lo firma el partido nacionalista vasco y eusko alkartasuna que forma parte de su coalición eusko alkartasuna firmaba esto hace tres años

de lo que son ustedes pero en todo caso la incoherencia de decir que esa frase puesta en esta proposición no de ley significa no solo una imposición sino que es una frase cruel el plantear que se defienda la lengua materna que es una conquista social en los últimos años que usted diga que es una frase cruel y que representa la imposición

desde luego la imposición sí que forma parte del pasado

que no respeta la voluntad de los vascos y eso es lo que vamos a defender en esta nueva etapa

terminar ya con las imposiciones y no desde luego venir aquí hacer frases gruesas y desde luego a practicar

a su propuesta el parlamento vasco insta al departamento de educación política lingüística y cultura a continuar en las haurreskolak con el tratamiento educativo asistencial de los centros favoreciendo desde el respeto a la lengua de origen señora ubera

y cumpliendo todos los fines para las que fueron creadas teniendo siempre como objetivo principal que los niños y niñas se sientan a gusto y bien acogidos

que ha estado apoyando a este gobierno al gobierno anterior quiero decir da la casualidad de que no se fía del gobierno al que apoyo y si se fiá en una propuesta ahora de compromisos no se sabe dónde

mire usted el respeto a la lengua de origen no quiere decir otra cosa más que se puede trabajar efectivamente en el euskera pero siempre obviamente

de la lengua de origen del alumno origen señora ubera que es en este sentido y en este debate lo mismo lengua de origen ele uno

en sentido amplio y naturalmente que se trabaja con respeto a la lengua de origen y el que no lo hace es porque no es buen profesional porque el buen profesional puede estar trabajando

en euskera porque esas criaturas van a ir sobre todo fundamentalmente

por la elección de las familias no por la imposición si no por la elección de la familias pero desde luego teniendo en cuenta su lengua de origen la lengua de origen hay que tenerla en cuenta siempre para trabajar profesionalmente

a estas alturas del curso usted de inspector después de todo el tiempo que hemos tenido para poder hablar de lo que se estaba haciendo en las escuelas infantiles

y señora ubera y todo el grupo mire usted con el fundamentalismo lingüístico

a ninguno absolutamente a ninguno el ochenta por ciento de los vascos y vascas señor oyarzabal tenemos como lengua de origen el castellano tenemos como lengua materna el castellano y solo por un deseo democrático por voluntad democrática

de esta sociedad queremos que todo el mundo

pero es la voluntad democrática no la imposición la voluntad democrática una y otra vez manifestada por esta cámara y por esta sociedad vasca y por eso vamos al bilingüismo y por eso trabajamos por el bilingüismo pero siempre

sí gracias presidenta recupere señora celaá guerrero creo que vendrá bien al conjunto de la cámara como ha hecho en esta segunda intervención creo que

no se ponga de perfil es importante este asunto y estará efectivamente encima de la mesa no solamente hoy sino posiblemente en las próximas semanas

en los próximos meses no podemos bajar la guardia no podemos dejarlo todo por perdido hay mucho que avanzar efectivamente hay mucho que avanzar en ese es el avance real que necesita euskadi más

imposición más parlamentarios democráticos y menos parlamentarios que defienden la imposición y en concreto la imposición lingüística eso es lo que defiende upyd y lo mejor para euskadi es ciertamente curioso

eh b pues vea en esta transaccional nada menos que crueldad imposición

hay que respetar en todo caso la lengua materna de los niños y niñas es decir respetando en todo caso el deseo de los padres y las madres es decir respetando la lengua de origen y ustedes consideran esto una imposición la imposición es lo suyo en todos los órdenes pero especialmente en el lingüístico

lingüístico la imposición del euskera la marginación del castellano la vulneración

de derechos lingüísticos ustedes han venido aplicando y defendiendo durante años políticas de imposición lingüística que efectivamente el partido socialista de euskadi y el partido popular durante los tres años y medio anteriores no modificar y en base a esas políticas lingüísticas en base a esa legalidad vigente ustedes siguen tratando de imponer el euskera

allí donde gobiernan esa es la realidad de los hechos podemos recordar perfectamente

lingüístico el fascismo lingüístico que bildu aplica allí donde gobierna

fascismo lingüístico impidiendo por ejemplo que determinadas empresas puedan acceder a concursos públicos ese es su modelo el fascismo

lingüístico y por lo tanto el resto de grupos el resto de grupos lo que tenemos que hacer es defender lo que tenemos que hacer es defender la libertad eso es avanzar defender

no menos efectivamente ustedes están aplicando en la diputación foral de gipuzkoa el fascismo

lingüístico esa es la realidad y nosotros y nosotros no sé si en solitario o acompañados vamos a defender más

ríase usted todo lo que quiera vamos a defender más libertad no sé si solos o acompañados

gracias presidenta a pesar de que hay un acuerdo
amplio respecto a la transaccional que finalmente hemos voy a alargarme unos minutos en la explicación de esta iniciativa y también en la explicación de esta transaccional que no es sino un punto de partida un nuevo punto de partida para poner deberes

respecto a esta cuestión de modo que de ahora en adelante el resto de grupos y en concreto el nuestro

controlar al gobierno y las actuaciones en esta

de esta transaccional que hemos firmado con el grupo socialista con el grupo nacionalistas vascos y con el grupo popular a los que lógicamente agradezco

tal como se explica la justificación de la iniciativa con la que pedíamos inicialmente la elaboración de un plan para el redimensionamiento y la racionalización del sector público vasco el partido que sustenta al gobierno vasco en el documento de trabajo que presentó al resto de formaciones políticas presentes en este

lo siguiente además y en el ejercicio de su propia responsabilidad el próximo gobierno vasco en la búsqueda de su propia estabilidad y equilibrio adquiere los siguientes compromisos

el punto cinco relativo a la racionalización del entramado institucional sociedades públicas organismos autónomos y entidades participadas además la reducción del entramado empresarial público vasco fue también uno de los propósitos

gobierno vasco y tres años y medio después los avances producidos en este campo pues ciertamente han sido muy escasos muy insatisfactorios por no decir

hace dos meses y defendemos hoy una nueva iniciativa parlamentaria para

del sector público vasco que debería implicar finalmente un redimensionamiento fusión o cierre de aquellas empresas públicas semipúblicas

los servicios públicos que necesitan los ciudadanos esta es la cuestión fundamental esta iniciativa tiene yo creo dos características fundamentales pedíamos la elaboración de un plan por parte del gobierno vasco que se ha presentado en el parlamento vasco quizás finalmente pueda ser una estrategia no le damos

y por otro lado la ausencia de un porcentaje específico en esta propuesta el gobierno es cierto que hablaba inicialmente de un veinte por ciento nosotros pensamos que puede ser mucho más pero en todo caso eso habrá que a pesar de que algunos grupos durante mucho años lo han venido negando permanentemente creo que se ha demostrado sobradamente que muchas de estas entidades no tuvieron otro objetivo en el momento de su creación en fin seguramente cuando al parecer sobraba dinero público

intereses de los partidos políticos que las impulsaron en lugar de ser un instrumento eficaz y eficiente al servicio del conjunto de los ciudadanos vascos

en ocasiones se crearon para soslayar los controles más estrictos a los que está sujeta la administración general y en numerosas ocasiones para actuar sobre materias en las que no se tenía competencia directa

competencias impropias en muchos casos han supuesto y siguen suponiendo competencia desleal a la iniciativa privada muchas de estas empresas

a los intereses generales de la ciudadanía no han incentivado ni incentivan la actividad económica no han ahorrado ni ahorran costes sino todo lo contrario no han aportado ni aportan valor añadido a los poderes públicos vasco no sirven en definitiva para que los ciudadanos

al contrario se han convertido muchas de ellas en gasto superfluo en rémora para el crecimiento económico y en nido de amiguismo y opacidad

un asunto esencial para alcanzar una administración pública más transparente más moderna más eficaz más eficiente y menos costosa nosotros durante los últimos cuatro años

cuestión como todos ustedes saben y hemos presentado innumerables iniciativas parlamentarias

solicitudes de información documentada preguntas para respuesta escrita preguntas para respuesta oral interpelaciones mociones proposiciones no de ley etcétera mención especial merecen las respuestas del gobierno anterior a nuestras solicitudes de información documentada dando incluso en sus respuestas números diferentes de entes a mismas preguntas realizadas por nosotros mismos o por otros grupos es decir

cambiar esta realidad cuanto antes modernizarnos en definitiva tener una mejor administración más transparente el señor erkoreka habló de fusionar empresas con servicios comunes suprimir duplicidades y eliminar

nos importaba tanto que se aprobase una iniciativa u otra queremos que esto se haga de verdad cosa que no se ha hecho hasta ahora ese es el propósito fundamental

una iniciativa bastante amplia que finalmente ha sido transada con el resto de grupos y que tiene como objetivo redimensionar la tela de araña

que existen en euskadi quiero dejar bien claro que esta iniciativa

lo opaco el amiguismo lo superfluo lo innecesario y lo ineficiente

en ese sentido pensamos que esta transaccional que hemos firmado es un paso adelante y un paso en la buena dirección ya digo instamos al gobierno a presentar en este periodo de sesiones es decir en los próximos cuatro meses una estrategia para el redimensionamiento y la racionalización del sector público con el objetivo de reducir su estructura y gasto corriente así como el número total de entidades hasta su nivel óptimo ya digo no marcamos una cifra concreta el gobierno vasco por causas que no llegamos a entender marcó una cifra concreta del veinte por ciento y nosotros la pregunta que nos hicimos en cuanto escuchamos al señor erkoreka

ochenta el sesenta o el cuarenta y siete desde luego

que alcance su nivel óptimo con el objetivo de lograr una administración más eficiente moderna y transparente y queremos instar a hacer el mismo ejercicio

nos interesa a todos insisto esta iniciativa no ataca ni mucho menos lo público ataca

creo que podemos modernizarnos muchísimo y creo que esta iniciativa abre camino en ese

seguiremos muy pendientes de los pasos que da este gobierno en este asunto nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda

eskerrik asko yo niego la mayor esta propuesta lo que ataca directamente es a todo el sector público no es casualidad que haya interés en poner en la agenda política

el asunto de la supuesta ineficiencia de la administración publica vasca este al igual que otros asuntos relacionados con la función pública tratados directamente en esta cámara

y es evidente que cuando se pretende generar un debate sin datos sin contenido sin criterios demostrables y sobre todo con un objetivo prefijado anteriormente

medias verdades y defensa de intereses velados pero reconocibles aquí se está presentando primero la conclusión

conclusión es cierta y no solo es cierta sino también lo es necesaria

de la mesa el pnv hay que recortar un veinte por ciento pp psoe y upyd ayudaran y negociaran en qué

señalan los objetivos fijan los criterios y solo piden a otros que pongan nombre y apellidos a la intención política manifestada aquí para llevar a cabo los recortes la responsabilidad compartida pesa menos verdad y encima

mejor que mejor yo le puedo adelantar el título de su plan

poner en duda el conjunto de las administraciones públicas vascas con el fin de debilitarla y conseguir nuevas privatizaciones se lo regalo

beharko ditu alegia beti gertatzen dena y eso es lo que siempre ha pasado primero se pondrá en duda lo que realmente funciona y que presta un servicio público de calidad para eliminar ese servicio venderlo concederlo a los cercanos conseguir con ello un pésimo servicio para la ciudadanía y que encima sea la administración pública la que pague y soporte el peso de una nefasta gestión privada

presuntamente que existe dentro de la administración pública pero qué casualidad

con otra que ponga en duda los contratos con las empresas privadas

corruptelas sobrecostes etcétera habría que revisar las adjudicaciones a empresas privadas o también las subcontrataciones y externalizaciones por poner un ejemplo al azar en los casos de las grandes infraestructuras y en los contratos que generan quizás se deba conocer también

entre las constructoras y subcontratas y los propios adjudicadores o puestos a criticar a la administración pública solo lo vamos a hacer en lo que ha servicios se refiere

no estoy diciendo nada que no sea tan demostrable o tan poco demostrable

solo señalo a otro lado para demostrar la intencionalidad de este debate y la poca valentía que existe para abordar otros en definitiva aquí de lo que estamos hablando es de personas

compuesta por personas que realizan su trabajo y que dan un servicio público a la ciudadanía qué supone recortar un veinte por ciento o más para este servicio

eso significa en definitiva empobrecer a la sociedad vasca siempre lo mismo

denunciamos que lo que realmente se esconde debajo de toda esta literatura y de este debate es el deseo por el debilitamiento de la administración pública vasca

el conjunto de la administración no se concreta se hacen abstracciones con el fin de entrar con la tijera a toda la administración se pone en duda el funcionamiento y el trabajo de las y los trabajadores de la función pública hablando de si hay organismos que no funcionan que si se utiliza para beneficios de partido etcétera

y se mezclan a sabiendas del daño que se genera para el conjunto de las administraciones y de los servicios públicos

que debe ser consciente con quién se alía con su afán de conseguir consenso sobre el futuro de esta administración ya que el objetivo que persiguen otros es el del debilitamiento

y en eso debería saber en quién puede apoyarse para confrontar contra esos objetivos y en quién no claro siempre que no comparta el primero de los objetivos que he citado el del debilitamiento y que ya el señor erkoreka parece que ha confirmado con recortes en políticas públicas sanidad y educación

enfrente y esto que denunciamos ha quedado reflejado claramente en la enmienda de transacción que todos los demás grupos han firmado y que nuestro grupo no está claro que su vocación es la de recortar en derechos sociales enmascarándolo con terminología de gestión quieren una tecnocracia y en esa dirección nos quieren arrastrar y repito

del sector público y no solo de dinero que es en lo que todos ustedes quieren centrar el debate eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko mahaiburu andrea eguerdi on guztioi bueno yo por centrar un poco el debate porque yo creo que el portavoz del grupo eh bildu estaba un poco despistado

se trata de buscar la eficiencia la máxima eficiencia utilizando nuestro entramado institucional y es en eso en lo que nos hemos basado y esa es la

es en lo que va la enmienda transaccional que hemos alcanzado cualquier otro día si quiere podemos traer este debate que a mí desde luego me interesa me he interesado cuando he estado

y la utilización de los recursos propios de la administración y la puesta en valor de los trabajadores públicos quería decir que parece que hemos empezado esta legislatura con la voluntad

de la ley de territorios históricos y queremos confiar en que el gobierno traiga a la cámara la reforma

con tiempo suficiente para su debate y aprobación porque es la otra gran pieza del puzzle institucional y competencial que falta en la foto de este país y que nosotros trajimos aquí el mes pasado y esta cámara

podemos y debemos trabajar en buscar la máxima eficiencia del gasto público y los tiempos de crisis económica consideramos que son tiempos también de oportunidad para buscar nuevas fórmulas de cuestionarse todo

respuestas más eficaces que sin menoscabar los servicios públicos y sin menoscabar la atención a la ciudadanía que es a quienes nos debemos podemos hacerlo mejor

iniciativa y que hemos alcanzado el acuerdo tiene una primera parte en la que el gobierno actual repite un mantra que es que va a recortar o va a reducir en un veinte por ciento las estructuras de la administración los organismos autónomos y las sociedades públicas

a día de hoy solo conocemos la reducción de dos consejeros menos debemos de esperar a los decretos de estructura

el volumen de asesores podremos ver si ese veinte por ciento en la estructura de la administración se ha cumplido

al gobierno no nos han explicado en qué se va a traducir la reducción del veinte por ciento en los organismos autónomos y en las sociedades públicas y si se va a reducir

o si se va a reducir amortizando puestos de trabajo desde luego esperamos con sumo interés desde mi grupo el desarrollo de este objetivo del gobierno pero evidentemente cuando hablamos de racionalización y redimensionamiento

o de las estructuras estamos pensando en algo más quirúrgico y más profundo como lo que empezamos ya hacer en la legislatura pasada en dos departamentos que tienen un alto índice de empresas públicas y participadas así como también fundaciones estoy pensando en el departamento de industria y en el departamento de agricultura

sino también el número de cargos de libre elección y se redujo el número de empresas todo ello después evidentemente de hacer un estudio previo de los sectores y de sus competencias

ordenada planificada y coordinada en el seno del gobierno no sería bueno que cada departamento desde luego fuera a su aire o que hiciera caso omiso a esta tarea que parece que el gobierno

lo dejamos al gusto del gobierno pero a mí lo que desde luego me ha sorprendido es una respuesta que ha facilitado el lehendakari a mi grupo sobre este tema hemos preguntado a varios departamentos

que no se trata de una propuesta ni de un plan en firme sino que es una reflexión en el seno del gobierno y nos dice también que no tiene una valoración económica de la reflexión porque tienen que hacer un análisis está muy claro que no lo tienen muy claro dentro del gobierno el consejero

a esta cuestión por eso desde mi grupo vemos positivo el acuerdo que hemos alcanzado hoy en esta cámara con esta transaccional porque pedimos una planificación al gobierno es decir una reflexión y una planificación con unos índices que esperamos encontrar en dicho plan donde

y podamos alcanzar esa reducción no solo de las estructuras sino también del número de sociedades públicas porque se puede seguir la senda iniciada en la legislatura pasada hay margen y hay normativa en tramite en el seno del gobierno que pudiera facilitar la reducción de empresas y una mejor gestión en áreas muy importantes del gobierno dentro del gobierno evidentemente en la legislatura pasada se hicieron centralizaciones de servicio que se puede avanzar en esa línea

y se hicieron otras iniciativas que redundaron en un ahorro en el gasto corriente y que pueden también en esta legislatura continuar en esa senda

cuántas sociedades estaban participadas por el mismo gobierno y que el señor damborenea del grupo popular recuerda a veces en sus intervenciones con la entonces vicelehendakari idoia zenarruzabetia que también tenía dificultades para encontrar la foto de cuántas sociedades y funciones teníamos en el gobierno vasco

y está en tramite del gobierno ahora evidentemente habrá decaído una elaboración estábamos trabajando en el borrador de una ley del sector público una especie de lofage vasca donde se establecieran unos criterios para cuándo se debe de crear un organismo autónomo un ente público

pero a sabiendas del periodo de tiempo que llevaba la elaboración de una ley y para tratar de clarificar

de su sector público adoptamos un acuerdo de consejo de gobierno en el cual ubicábamos en la oficina de control económico un registro de todas esas entes sociedades

el calendario legislativo de este ejecutivo para ver si esa ley se encuentra

legislativo desde luego lo que también recoge esta iniciativa de hoy esta enmienda transaccional es el trabajar por abordar estas mismas preocupaciones y esta misma inquietud que vamos a trabajar a nivel de administración

y en los ayuntamientos saber quién hace qué y con qué recursos y también ser más eficientes

tenemos las mismas cosas que hacer o muy parecidas y por lo tanto se pueden encontrar muchas sinergias

entre todos es por eso por lo que le solicitamos al gobierno que lidere una estrategia o que lidere conjuntamente con eudel y con las diputaciones aquellos sectores en los que son comunes y se pueden abordar las de manera común

de hacer cada uno lo nuestro y nos olvidamos del resto y entonces nos encontramos con una réplica que puede ocurrir dentro del propio gobierno vasco pero evidentemente ocurre en la comunidad autónoma en las administraciones y por lo tanto hay campos como puede ser el de la tecnología

el tema de la promoción económica o pueden ser otros campos donde se puede buscar la máxima eficacia y la máxima eficiencia en el entramado público y servir mejor a los ciudadanos porque con el dinero que nos ahorramos podemos incrementar servicios hacerlos mejor o pensar cómo los hacemos mejor porque por ejemplo en el campo de las tecnologías existen cuatro empresas informáticas en euskadi cada diputación

todas haciendo lo mismo y todas enfrentándose a las mismas necesidades por lo tanto

y yo creo que en ejemplos como ese concreto que acabo de poner se pueden seguramente encontrar sinergias con las otras administraciones

de lo que estábamos hablando cuando se había planteado esta proposición no de ley pero parece que algunos no se han enterado o da lo mismo de lo que se hable

pero este si es un asunto muy viejo porque yo recuerdo que hace unos veinte años este tema ya estaba planteado sobre la mesa y en este parlamento y yo recuerdo que siendo vicelehendakari el señor ibarretxe

primero para ver si la estructura que rodeaba la administración del propio gobierno vasco estaba sobredimensionada o no y también recuerdo que después de dos años de informe de la corame y unas cosas así se llegaba a una conclusión que es que había una sociedad

y recuerdo que nuestro grupo preguntó en comisión y qué vamos a hacer la cerramos no le cambiamos el objeto social

cinco seis siete ocho veces el número de sociedades públicas semipúblicas

porque solo el cincuenta por ciento del capital social era del gobierno vasco y el otro cincuenta por ciento era de otras administraciones públicas las cuales como eran

estaban al margen de cualquier control parlamentario del parlamento vasco o de las propias juntas generales o de los propios ayuntamientos hasta el punto de que hace unos diez años

y demás organismos en los que participaba el gobierno vasco el gobierno vasco fue

incapaz de decir en cuántos participaba y nos mandó una relación de más de cien al que le faltaban por lo menos otros cuarenta

de qué estábamos hablando y yo supongo después de oír los discursos que estoy oyendo esta mañana de eh bildu y esto de la suficiencia alimentaria

cosa que para nosotros no era una prioridad social de ningún tipo de ningún tipo

aparte de una filial que es que exportaba los huevos también si

intentando racionalizar un poco el gasto nosotros sí nos ocupamos de las personas pero de todos los vascos de los que todo esto se hace a costa de su dinero y en fin nosotros pensamos que cuanto mejor se use el dinero de todos los vascos y mejores servicios se den a todos los vascos desde luego nosotros no estamos pensando

entraron a dedo siguen a dedo y no se sabe que hacen en muchos casos

si alguien se refiere a personas y hay que pensar en las personas

que les pagan a esos que somos todos los demás vascos y por lo tanto pues este que es un tema recurrente en esta cámara desde hace unos veinte años a lo mejor alguno que acaba de llegar piensa que estamos hablando de los funcionarios no estamos hablando de unas cosas muy concretas y unas sociedades muy concretas

algunos más de veinte años y hace muy poquito hemos conseguido que algunas de las sociedades participadas tengan que rendir cuenta de algo incluso en este parlamento

empresas privadas pese a que el cien por ciento del capital sea público nosotros habíamos presentado la enmienda diciendo que nos parece muy bien que este gobierno también entre sus intenciones iniciales esté racionalizar todo el entramado público vasco nos parece muy bien y nosotros lo que habíamos y ya tomándole la palabra al propio gobierno de la reducción del veinte por ciento

por qué porque reducir el veinte por ciento la estructura no implica que se reduzca el gasto corriente es más incluso lo puede incrementar

en la enmienda transaccional ya se habla de reducir la estructura y el gasto corriente cosa que no venía en la enmienda del propio gobierno

daremos una legislatura más el beneficio de la duda de si de verdad esta vez conseguiremos racionalizar de una vez todo el entramado público vasco no solo el del gobierno el del gobierno el del gobierno con las diputaciones

y el del gobierno con otras instituciones porque de todo hay de todo hay y repito que

peculiar vamos a decir peculiar que veinte años después seamos incapaces de poder decir que una sociedad anónima

públicas o de varias de ellas funcione como una entidad privada y al margen de todo tipo de reglas que rigen

y de las administraciones públicas debieran por lo menos dentro de lo que yo puedo entender

estar de acuerdo con eso y evidentemente supongo que estamos todos aquí para intentar que los mayores beneficios que son todos los ciudadanos que nos han votado

de esta reforma que vamos a darle el voto de confianza una vez más también a este nuevo gobierno como se lo dimos al anterior y como en su momento también se lo dimos

eta horien artean azpimarratu zuen lehendakari izanez gero eusko jaurlaritza murritzagoa izango zela el lehendakari dijo que el gobierno vasco que fuera a presidir sería más ajustado

y que para ello propondría simplificar también la red de sociedades y organismos públicos

pero el proceso iniciado no termina ahí cada departamento está trabajando para dotarse de una estructura más ajustada con la consiguiente reducción de altos cargos y de personal asesor eventual por lo tanto como primer paso tenemos que el lehendakari ha conformado su primer gobierno con ocho consejeros

asimismo el lehendakari planteó la necesidad de reordenar y simplificar la estructura del sector público dependiente de las sociedades públicas y organismos públicos de la comunidad autónoma y asumió el compromiso de que la reducción de esta estructura

sin embargo en la enmienda acordada hoy no hacemos referencia a porcentajes concretos porque creemos que es muy difícil poder calcular exactamente cuál es el porcentaje idóneo pero sí manifestamos

llevar a cabo el ajuste necesario para que la administración del sector público vasco sea la más eficiente moderna y transparente posible principios que compartimos plenamente halaber uste dugu

hemos llegado a un acuerdo porque entendemos que el lehendakari y su gobierno están plenamente comprometidos en relación con las ideas recogidas en la enmienda que hemos acordado finalmente de hecho

ha ratificado recientemente la intención de llevar a cabo un plan en este sentido

las estructuras de la administración institucional y empresarial del sector público

según el portavoz del gobierno vasco el gobierno está trabajando para reducir el número de sociedades públicas y de altos cargos dependientes de estas y todo ello

la educación o las políticas sociales por lo tanto se incide en la idea de que el objetivo es maximizar la eficacia sin perjudicar los servicios que prestan estas entidades

entre otros por tanto los objetivos a conseguir con este plan serían evitar actuaciones dispersas

y todo ello para lograr la unificación y complementariedad de empresas que presten servicios comunes y para procurar reestructuraciones que produzcan un ahorro de costes en este sentido

se aprobó la modificación reglamentaria que posibilita suprimir la intervención de osakidetza

de esta forma se prevé la creación de un nuevo servicio que dará cobertura al ejercicio del control financiero permanente

este es un ejemplo más esta medida incrementa la eficiencia en la gestión de recursos humanos de los que se disponen sirve para adecuar la labor de la oficina de control económico a la actualidad de la realidad de la administración

sean controladas con la continuidad inmediatez y especialización que la actual coyuntura económica requiere además se ajusta a las medidas de reducción de estructura previstas

sí gracias presidenta de manera breve porque creo que todos los portavoces que sabemos perfectamente de lo que estamos hablando estamos básicamente

o deberíamos estarlo con el objetivo de esta transaccional en fin el representante de hb únicamente decirle que se ha equivocado de debate

que se mantienen detrás de esa administración paralela y de esas sociedades inútiles que nosotros queremos reducir hablan de tijeras hablan de privatizaciones hablan de recortes de derechos sociales habla de tecnocracia

que es de la españolización que significa esta no es nada de eso ni tampoco es españolización porque precisamente en el resto de españa también existe este problema es algo característico de españa desgraciadamente la acumulación de entes empresas públicas semipúblicas fundaciones que nadie sabe exactamente para qué sirven salvo para colocar

o para que haya más jefes que subordinados incluso en algún caso por lo tanto el objetivo de esta iniciativa es conseguir una administración eficaz

que derrochamos en estos asuntos se destine a lo importante al estado del bienestar a la sanidad a la educación este es el objetivo conseguir por lo tanto unos mejores servicios públicos y esto es lo que pretendemos efectivamente

un nuevo punto de partida como decía el señor damborenea esto se debatía ya

muchísimos años esperamos que este gobierno dé pasos en este sentido esperamos que la crisis brutal en la que nos encontramos ayude

para hacer lo que se tenía que haber hecho hace muchísimo insisto esta iniciativa no ataca en absoluto lo público sino más bien todo lo contrario queremos tener una administración mejor más eficaz y más transparente en fin creo que no merece la pena decir mucho más estamos todos básicamente de acuerdo nosotros en todo caso

con esta que podremos debatir y que ya se debatió en la pasada legislatura que tiene como objetivo algo que yo creo que es muy importante especialmente en los tiempos que corren y es que ciudadano pueda a través de la web acceder a toda la información relativa a todas estas empresas públicas entes fundaciones sepan

qué puestos de trabajo hay cuántos jefes hay etcétera creo que es el derecho que tienen los ciudadanos de conocer todo esto perfectamente por lo tanto

mejor para los ciudadanos servir mejor a los ciudadanos y por otro lado que va de la mano conseguir que esa administración sea muchos más transparente efectivamente vigilaremos al señor erkoreka y a su gobierno para que estos objetivos puedan cumplirse gracias

lo que quería con la intervención era poner y generar otro debate que en esta cámara por lo menos parece que no es tan interesante

de los contratos que genera la administración pública bien pocas veces se habla y de cómo se revisan esos contratos posiblemente no hablaremos nunca

cuántos hay cuántas cosas están pasando que luego no pasan ni se preguntan pero en esto sí perfecto euskal herria bildu defiende la administración pública y somos los primeros que hemos defendido también y nos hemos puesto en contra de lo que son las empresas públicas

y qué personas están en esas gerencias también lo hemos sido nosotros sí pero que eso no signifique

donde realmente centramos finalmente la tijera que es la tijera la centramos en lo que es la administración pública y sino

para ahorrarnos cien millónes de euros qué realizó pues lo que siempre pasa recorte dónde se recorta

se recortan complementos por baja y eso es lo que pasa cada vez que se habla en esta cámara

entrar a recortar todos los entes públicos o todos los intereses públicos de los que se están hablando euskal herria habla de defender y preservar los derechos sociales y dar un futuro a este país y eso no se hace ni recortando ni privatizando los servicios públicos de calidad dan soporte a los derechos de la ciudadanía

es dejar sin contenido los derechos y eso que quede claro porque aquí siempre luego volveréis a decir que es porque soy nuevo porque no me he enterado del debate pero aquí cada

quién paga es otro pero sigue habiendo las mismas empresas ustedes mismos lo han dicho

conclusión o no ha servido para nada o realmente cada vez lo que se está tocando y es siempre lo mismo son las y los trabajadores del sector público porque las empresas ya vuelvo a repetir

centremos también el mismo debate al señor damborenea

que lo que quiere es que el servicio público sea de calidad de calidad para quién

ustedes que no tienen empresas públicas semipúblicas y demás en todo el resto de españa está diciendo que aquí lo que está haciendo es simplemente

partidistas que se han creado me está diciendo en serio

le iba a decir la cara pero sí la cara de decirlo y al señor maneiro mire yo le creo

va a tener toda la credibilidad del mundo

es la de la administración pública española y lo denuncie también porque el sobre coste que supone también la administración pública con sus duplicidades y que tenemos que pagar también los vascos

y habrá que traerlo también a esta cámara y en ese debate también estaremos nosotros eskerrik asko eskerrik asko lópez de munain jauna euskal sozialistak taldearen

a ver yo creo que tienen que ser ustedes conscientes de que la política de pancarta da de sí lo que da de sí y sobre todo te da de sí cuando no gobiernas ningunas institución

y el ayuntamiento de san sebastián en dichas instituciones evidentemente han hecho ustedes ejercicio de contención del gasto de personal sin menos cabo espero nosotros desde luego abordamos el gasto de personal cuando estamos en la responsabilidad de gobierno

de todo el empleo público de hecho cuando llegamos al gobierno nos encontramos con una interinidad del treinta y tres por ciento y la hemos dejado en la mitad y hemos hecho ofertas públicas de empleo incluso contra el criterio del gobierno de españa pero convenciéndoles finalmente para que fuera un empleo público de calidad y seguro para las personas de este país porque creemos en los servicios público pero lo que no puede ser es que venga usted aquí primero se confunda de debate

que ustedes no cumplen pregunten a sus compañeros del ayuntamiento de san sebastián y de la diputación de gipuzkoa en fin

hace falta tener para hacer una primera intervención y que se le tenga que decir a uno que de eso no hablábamos

oiga pues plantéelo cuando quiera plantéelo cuando quiera si en su grupo

de hablar del entramado societario público vasco

de los recortes sociales traigan una proposición no de ley sobre los recortes sociales si quieren hablar de las privatizaciones traigan una propuesta

en su grupo quién es tan optimista de pensar que si en este país privatizáramos alguna de las sociedades públicas que tenemos alguien la iba a comprar

y si usted quiere hablar de la privatización de la sanidad háblelo pero tampoco lo confunda con la concertación de la sanidad ni de la educación

la próxima vez que quiera usted hablar de algo plantéenos la iniciativa sobre lo que quiere hablar entérese de lo que quiere hablar de qué va el tema y no nos haga perder el tiempo a los demás muchas gracias

y que un partido que públicamente dice que no apoya a los despidos lo hace

utiliza las mismas justificaciones que la empresa privada a la hora de llevar a cabo despidos

pero que la situación económica le obligaba a tomar decisiones urgentes